la reforma vehiculizada por la ley orgánica siete barra dos mil tres de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas

evitando todo tipo de redenciones o revisiones de condena o lo que es lo mismo remitirlos al cómputo total de la pena lo cual equivale

a una reclusión a perpetuidad este es uno de los modelos más evidentes de justicia retributiva de imposición de una pena

de castigar por una voluntad de revancha por una voluntad de venganza es la redición de la antigua ley del talión

es la imagen viva del derecho penal del enemigo ese que no se aplica a ciudadanos a personas sino que una vez oportunamente deshumanizados se aplica a enemigos tras una oportuna campaña en la que excitar los sentimientos más bajos de la ciudadanía exaltar estados de alarma o situaciones de inseguridad se puede imponer una pena carente de objetivo

un castigo sostenido en sentimientos de revancha lejos del principio que la propia constitución instituye en las penas para la rehabilitación y

también del preso político de esos polvos estos lodos bi mila hiruan erabakitako zigor berri horiek etorkizunean

beste urrats bat había urgencia había emergencia por aplicar aquellas medidas penales severas por lo que se recurrió

por la doctrina ciento noventa y siete barra dos mil seis más conocida después como doctrina parot esta interpretación introdujo una fractura

democrático y de derecho aplicando con retroactividad el cumplimiento de condena en términos más severos más perjudiciales para el preso a los impuestos

una nueva cuantificación de su pena cuando además se encontraban a las puertas de ser liberados una nueva interpretación de la condena que afecta de forma irreversible irremisible

tenía de acceder a su derecho

esa trampa ese fraude de interpretación vulnera el convenio europeo de derechos humanos y sobre la base de sus artículos cinco y siete

contra españa el artículo cinco de la convención

y el artículo siete que bajo el título de ninguna pena sin ley explicita que no podrá ser impuesta una pena más grave

en el momento en que la infracción haya sido cometida o lo que se conoce habitualmente

retroactividad de decisiones o interpretaciones desfavorables para el preso o presa en consecuencia estrasburgo emitió

una sentencia unánime una sentencia potente una sentencia bien fundada que instituía

el espíritu de los cambios legislativos realizados después de la comisión de la infracción y que además incluía un mandato imperativo expreso al gobierno de españa la inmediata rehabilitación

del río no aceptar el carácter vinculante inmediato de una decisión del tribunal europeo de derechos humanos es un verdadero escándalo la audiencia nacional hizo oídos sordos a esta decisión jurídica de obligado cumplimiento

soportado más en cuestiones meramente voluntaristas en cuestiones de oportunidad política más que en razones jurídicas

por la excepcional trascendencia y la extraordinaria relevancia social

podía tener presuntamente en españa nuevamente se intenta incitar bajo sentimientos para buscar una decisión no

en el nuevo proceso que se celebrará el próximo día veinte si el gobierno español quiere revocar la decisión del tribunal europeo de derechos humanos sobre él

estiman las naciones unidas las penas de prisión superiores a quince o veinte años provocan daños irreversibles en la personalidad del penado por lo que establece en el principio de que una pena superior a quince o veinte años

como una pena inhumana o degradante el cumplimiento de veinte treinta o cuarenta años en prisión sin posibilidad de beneficios penitenciarios permisos

se presenta incompatible con el principio de reinserción social de resocialización

flagrante violación del derecho de igualdad y libertad

gracias presidenta buenos días a todos obviamente votaremos en contra de esta propuesta de eh bildu lo cierto es que

vuelven a hablar de presos políticos que es una forma de justificar las acciones criminales de eta por lo tanto eh bildu hoy otra vez en el parlamento vasco vuelve a justificar

criminales de eta no hay presos políticos en españa lo que hay son presos que están en las cárceles

no hay presos políticos y quien diga que hay presos políticos lo que está haciendo nuevamente otra vez aquí en el parlamento vasco es justificar las acciones criminales de eta eh bildu hablando

el colmo del cinismo insulto a la inteligencia insulto a la democracia insulto a los ciudadanos vascos eh bildu

a insultar a la sociedad democrática vasca una formación política que no condena a eta pretende con su discurso justificar

criminales y sus daños irreversibles esto sí que son daños irreversibles y sus acciones degradantes y crueles estas sí que son acciones degradantes y crueles justificar por lo tanto es lo que hace eh bildu justificar las acciones

una organización terrorista todavía viva que asesinó

mujeres y niños y otra vez eh bildu vuelve a justificar

al decir que hay presos políticos en españa

nosotros defendemos el mantenimiento por lo tanto de la doctrina

porque no puede ser lo mismo haber asesinado a dos personas que a veintiuno por lo tanto defendemos el mantenimiento de la doctrina parot por ser justa porque estamos en contra de la tarifa plana para los asesinatos de eta que es lo que viene a reclamar eh bildu

proponemos que este parlamento apoye al gobierno de españa

relativo a la aplicación de la denominada doctrina parot por considerar la citada doctrina garante de justicia

de terrorismo es una doctrina no es una ley es una interpretación que cada gobierno tiene derecho a hacer y nosotros apoyamos por lo tanto esta interpretación y apoyamos sin ningún tipo de dudas la doctrina parot por justicia

nuestra enmienda de totalidad demos algunos datos interesantes la justicia francesa condenó en dos mil cuatro

sin llegar a herir a ninguno de ellos fue condenada a diecisiete años de cárcel observemos algunos datos en españa mercedes galdós

después de cumplir diecinueve años de cárcel estaba condenada por trece asesinatos de juana chaos hubiera sido puesto en libertad tras dieciocho años de prisión

por unos artículos publicados en gara estaba condenado por veinticinco asesinatos enrique letona viteri

estaba condenado por diez asesinatos unos meses después

porque se dieron cuenta de que tenía más sumarios pendientes de juicio lo han condenado en más casos y ahora sigue en prisión pero ya había quedado libre por los diez primeros asesinatos

fue condenado a más de setecientos años de cárcel salió en libertad

dieciséis años varios atentados y tres asesinatos domingo

hubiera salido después de diecinueve años de cárcel tiene los veintiuno asesinatos de hipercor a sus espaldas y tres asesinatos más

jainaga condenado por ocho asesinatos hubiera salido después de veintitrés años si no se le aplica

henri parot hubiera salido en dos mil once después de cumplir veintiuno años por treinta asesinatos si no le hubieran aplicado la doctrina parot en francia

por participar en las mismas actividades los dos fueron detenidos a la vez uno en españa y otro en francia los tribunales franceses han rechazado las peticiones de libertad de jon parot que tiene cadena

condenada por veintitrés crueles y degradantes asesinatos a la que eh bildu defiende con ahínco y al parecer con fondos propios un caso especial el caso de josé ángel

del comando oker condenado a más de cien años de cárcel por tres asesinatos salió a los dieciocho años este es joxean agirre que acaba de ser elegido miembro de la dirección

si tanto les gusta lo que dice estrasburgo pueden empezar los miembros de eh bildu

señalaba que la falta de condena era suficiente para ilegalizar a un partido político a día de hoy amaiur bildu eh bildu siguen sin condenar las acciones criminales de eta en conclusión

justa y necesaria porque estamos en contra de la tarifa plana para los asesinatos de eta no puede ser lo mismo asesinar a una persona que a diez

por lo tanto la aplicación de la doctrina parot es una cuestión

y nosotros la apoyamos sin ningún tipo de duda muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jauna

lo primero que quiero en nombre de los socialistas vascos es dejar claro para deshacer falacias e interpretaciones que solo pretenden cambiar la realidad

es que no estamos hablandode presos políticos como dice el representante de eh bildu estamos hablando de presos terroristas la doctrina antiterrorista

no se ha aplicado a presos políticos vascos como dice el señor arzuaga en su escrito sino que se aplica a terroristas

asesinatos cometer atentados o formar parte de eta y esto es muy importante dejarlo claro desde el principio porque si no una vez más estaríamos aceptando

porque por mucho que se empeñen y se empeñan todos los días la realidad es tozuda y no se va a rescribir la historia en este país ha habido gente que asesinó y gente que fue asesinada

que amenazaba y extorsionaba y gente que era

había gente que se oponía a la estrategia totalitaria de eta y otros que la aplaudían incluso había gente

o que defendían la estrategia de socializar el sufrimiento han cambiado

pero la historia es la historia y no se puede falsear hemos conseguido acabar con el terrorismo

y todos tenemos que estar dispuestos a mirar al futuro también también juntos construir el futuro pero cada uno asumiendo las responsabilidades de su pasado dicho esto

es una iniciativa más de agitación y propaganda una iniciativa destinada a meter ruido o a presionar a los

es una iniciativa más para alimentar a su propia parroquia que una iniciativa que quiera buscar soluciones es

y falsedades que desde luego los socialistas no podemos aceptar porque

la decisión del tribunal de derechos humanos de estrasburgo porque ese tribunal lo que hasta ahora

presentada por una terrorista inés del río pero en ningún caso esa sentencia es firme porque el gobierno de españa la ha recurrido y nosotros

en el ámbito español y también en el ámbito internacional pero también asumimos los tiempos de la justicia también asumimos

como en este caso y esperamos que eh bildu que ahora hace gala y apela permanentemente a la justicia y a las decisiones de los tribunales

los tribunales porque hasta ahora ese comportamiento no lo han tenido ustedes en todo caso es evidente

y que el mundo de batasuna que tradicionalmente le dio cobertura y apoyo

estamos en un nuevo tiempo y es verdad que muchas cosas han cambiado en euskadi y es cierto

y trabajar primero para hacer irreversible el final del terrorismo para que eta desaparezca y también para poner las bases y asentar la paz la libertad y la convivencia y los socialistas vascos

estos objetivo pero dejando claras las cosas desde el principio

nosotros hemos defendido que tiene que ser una política dinámica y flexible que permita que los presos de eta también los presos de eta en el marco de la legalidad y cumpliendo esta legalidad puedan avanzar en el camino de la reinserción lo hemos dicho en muchas ocasiones

celebrado en este parlamento el ocho de marzo del año pasado y hoy aquí volvemos a reiterar nuestra posición con una enmienda a la totalidad

hemos presentado además esta enmienda a la totalidad porque no compartimos ni la forma ni el fondo de su iniciativa porque como ya he dicho la sentencia

de que sea firme porque ha sido recurrida por el gobierno de españa y será dentro de poco el próximo veinte de marzo cuando el tribunal se pronuncie definitivamente sobre el fondo por eso no se entiende ni política ni jurídicamente que se intente hacer extensiva

y simplemente lo que se está queriendo hacer es poner el carro delante de los bueyes nosotros tampoco compartimos

una iniciativa que forma parte como digo de esa estrategia perfectamente orquestada

mociones en ayuntamientos y en otras instituciones que solo tiene como objetivo movilizar

a ustedes las decisiones de la justicia les importan poco desde luego afectan en pocas ocasiones la separación de poderes pero

de una sentencia que en absoluto tiene aplicación en estos momentos

partidarias porque si ustedes quieren hablar de derechos humanos hablemos de derechos humanos pero no sean selectivos porque hablan de derechos humanos

sobre las décadas que eta asesinó que cometió atentados

ni una palabra ustedes tienen una doble vara de medir para actuar

y desde luego no le preocupa la legalidad le preocupa simplemente que algunas sentencias de los tribunales le den a ustedes la razón en su estrategia

ustedes saben que el futuro de los presos de eta está en manos de los presos de eta

en manos de lo que ustedes decidan políticamente porque yo les animo a que no solo faciliten sino que apoyen y animen a los presos de eta a acogerse a la legalidad penitenciaria

el camino está muy claro primero que los presos condenados

a eta rompan definitivamente con eta reconozcan el daño causado muestren su voluntad de recorrer el camino de la reinserción está en manos de los presos de eta poder reinsertarse poder acogerse a los beneficios penitenciarios

y no impedir como hasta ahora ese camino estoy convencido que la desaparición definitiva de eta tiene que abrir pasos para un nuevo tiempo en el que podamos ir abordando cuestiones tan importantes como esa por eso nosotros

primero en la que se recoge que lo prioritario

aquí tienen ustedes señorías de eh bildu una nueva oportunidad para sumar sus votos en esa reclamación

planteamos como ya he dicho que todos animemos a los presos de eta a romper con la banda terrorista a alejarse de la violencia a cogerse y respetar la legalidad

la misma legalidad que ustedes se han acogido para estar sentados en esos escaños

y por último también dos cuestiones importantes como ya he dicho una política penitenciaria que en el marco de la ley sea

en una política de reinserción y que todos instituciones organizaciones políticas y sociales aceptemos siempre

a todos empezaré diciendo

que como muy bien se ha dicho aquí la

modificó el criterio jurisprudencial en el cumplimiento de las penas a traves de como se ha dicho aquí también la conocida doctrina

que posteriormente fue confirmada por el tribunal constitucional en numerosas sentencias mediante esta resolución judicial el tribunal supremo

sino que lo que hacía era que las redenciones de la pena por beneficios penitenciarios no debían descontarse del tiempo máximo de estancia en prisión sino que la reducción se debería aplicar

de forma individual comenzando por aquellas de mayor cuantía se trataba como he dicho por lo tanto no de la aplicación de una nueva legislación sino una nueva interpretación del cómputo de los beneficios

tal y como ha puesto de manifiesto el tribunal constitucional como decía no nos encontramos por mucho que ustedes insistan en esa manipulación que siempre hacen en la aplicación de los tipos penales sino en el de la ejecución de la pena esta resolución resolvía el recurso presentado ante el tribunal supremo por el miembro de eta henri parot condenado

o lo que es lo mismo a cincuenta siglos y que iba a salir de prisión

menos de veinte años del total de su condena es cierto que la constitución en su artículo veinticinco orienta el cumplimiento de las penas hacia la reeducación y la reinserción social pero ello no significa que la reinserción sea el único fin de la pena

como la prevención especial y la prevención general y además también tener en cuenta la gravedad en los criterios retributivos de la pena por tanto la jurisprudencia tanto del tribunal supremo como del tribunal constitucional mantiene que las penas tienen una finalidad resocializadora pero también una finalidad aflictiva

armonizable como decía con otras finalidades de la pena y con la exigencia de justicia prevista y existe otro principio que preside la interpretación en esta materia

que descansa en que el autor de diversas infracciones cometidas debe cumplir por todas y cada una de ellos en caso contrario estaríamos dando el mismo trato punitivo al autor de un solo delito que al seriado criminal que tiene sobre sus espaldas un amplio historial delictivo y por lo tanto en los casos de múltiples asesinatos ese principio el principio de humanidad debe estar al lado de las víctimas

del cumplimiento humanitario de la condena y así lo ha establecido el tribunal supremo cuando señala que el establecimiento de límites máximos del cumplimiento de la pena no supone el olvido radical por parte del estado

no se puede como les decía señorías equiparar legalmente a quien ha cometido un solo delito con el que

y en aplicación de este criterio no es de recibo que terroristas no presos políticos vascos porque no están en la cárcel ni por política ni por ser vascos sino por haber cometido delitos terroristas como decía no es de recibo que terroristas como henri parot santi potros kubati o domingo troitiño condenados a cuatro mil setecientos noventa y nueve años a tres mil ciento veintidós a mil setenta y seis a novecientos años de cárcel respectivamente

por veintitrés asesinatos consumados y cincuenta y siete en grado de tentativa salgan de prisión habiendo cumplido una parte exigua de la condena impuesta

pero no solamente se aplica a terroristas porque no es de recibo tampoco que criminales como asesinos múltiples violadores

autores de múltiples delitos reciban el mismo tratamiento que los autores

y es cierto que el tribunal europeo

parot pero no es menos cierto que la resolución de dicho tribunal no ha adquirido firmeza ya que sus decisiones únicamente son definitivas

su dictamen y está recurrido por parte del gobierno

que ha presentado un recurso ante la gran sala siendo admitido a trámite dicho recurso y por lo tanto se debe esperar a su dictamen final bildu una vez más falta a la verdad a sabiendas

se transmitirá al comité de ministros que velará por su ejecución pero ese compromiso nace como decía a partir de la promulgación de la sentencia definitiva

todavía no lo es y no es menos cierto además que se podía haber exigido

se hizo fue sugerirla por ello al no ordenar esa ejecución provisional de su sentencia y en base al alto riesgo de fuga valorado por el propio gobierno

es por lo que se consideró adecuado mantenerla en prisión a la espera del fallo definitivo tampoco es cierto como usted ha dicho aquí que el gobierno de españa obvie total y absolutamente el tribunal de derechos humanos que obvie

que a pesar de que las sentencias del tribunal europeo son sentencias declarativas y así se ha dicho en múltiples ocasiones y por múltiples juristas a pesar de ello ha dicho

la cumplirá y además no es cierto

que se haya presentado por una motivación puramente política sino como decía y como se ha dicho aquí por entender que no se trata de una aplicación retroactiva de la ley

interpretación que entra dentro de las propias competencias de cada estado que es la legislación penitenciaria y ustedes señores de bildu una vez más realizan un ejercicio de cinismo político ponen en valor las sentencias judiciales en función

cuando dichas sentencias son contrarias a sus intereses no solo critican las mismas sino que tienden a desacreditar y deslegitimar al conjunto del sistema por el contrario cuando estas sentencias le dan la razón aunque sea parcialmente y provisionalmente

ustedes maestros en el ejercicio de la propaganda lo magnifican

que el gobierno que el partido popular que el resto de los partidos desde luego

pero y ustedes ustedes ahora que parecen ponen en valor a ese tribunal de derechos humanos a ese que a ustedes ahora apelan una y otra vez

punto por punto de manera rotunda y contundente la ley de partidos ley que ha servido para ilegalizar por ser parte de eta a todas y cada una de las marcas

y la última sentencia en este sentido se produjo recientemente cuando dicho tribunal avaló la ilegalización de anv utilizando frases tan clarificadoras

porque estaba en contradicción con el concepto de sociedad democrática

las reglas de la democracia y que busca su destrucción o que la disolución de anv perseguía el mantenimiento de la

la defensa del orden y la protección de los derechos humanos y las libertades del prójimo por tanto se avalan y conceden legitimidad en este caso a las resoluciones del tribunal de derechos humanos les quiero formular las siguientes preguntas consideran ustedes como ha expresado de forma rotunda y categórica dicho tribunal

han sido parte integrante de eta y son parte integrante de eta consideran ustedes que en base

que esas marcas ilegalizadas estaban al servicio de una organización terrorista avalan por tanto los dictámenes

marcas que dan legitimidad a las resoluciones previamente dictadas por los tribunales españoles y quiero terminar que además este asunto tiene una vertiente jurídica

ello exige un cumplimiento justo y proporcionado de las penas que acompañe al resarcimiento de las víctimas que es precisamente lo que persigue la doctrina

debe ir de la mano y debe terminar abrazando a la razón moral con el fin de evitar la desnaturalización y la degradación de nuestro sistema de garantías nosotros

porque ello sería una expresión de injusticia pero sí apostamos por una justicia

moral y con dignidad queremos por tanto una justicia que no provoque indefensión moral

porque ello nos degeneraría como sociedad democrática y luego me referiré a la manipulación del lenguaje y de los hechos

el parlamento vasco muestra su rechazo al cambio de criterio manifestado por el tribunal supremo en materia de acumulación y redención de penas impuestas conforme al código penal de mil novecientos setenta y tres cambio que viene a infringir los principios de legalidad de seguridad jurídica

individuales y solicita a los órganos instancias competentes que apliquen la normativa en el mismo sentido que lo venían haciendo

con la sentencia ciento noventa y siete barra dos mil seis

sortu desarrollará su actividad desde el rechazo a la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos

aipatzen du cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas beraz ezker abertzaleak pausoa eman badu

de este modo voluntariamente a las resoluciones del tribunal europeo en los términos que este establece es cierto que la sentencias no son obligatorias en su integridad pero resulta contradictorio que un estado firme un convenio y no cumpla las resoluciones de este tribunal

la irretroactividad de las leyes penales desfavorables si bien la corte europea admite y reconoce que los tribunales nacionales están mejor situados para interpretar y aplicar

no es admisible que el derecho penal pueda ser interpretado extensivamente

internacional pero en todo caso debe ser cumplido martxoaren hogeian europako auzitegiak espainiako estatuak jarritako helegitea erantzun beharko du

la historia es la historia y no se puede falsear la historia del conflicto

y su solución será de raíz política hay presos políticos

y hay políticas excepcionales que se les aplica a un colectivo concreto sistemáticamente políticas siempre

gutxi dela esan den bezala parte exigua de la pena que se cumple

consideró la cadena perpetua incluso más aflictiva que la propia pena de muerte ha habido resoluciones y ha habido resoluciones del tribunal europeo de derechos humanos pero también de otros órganos las naciones unidas se han acercado al caso

se ha adentrado en una pendiente resbaladiza en materia antiterrorista

el agravamiento de las penas y a menudo también la modificación de las normas relativas al cumplimiento de las penas una interpretación

valor de decisión emitida por un

al cual a su mandato se somete el estado español se comenta que algunas penas

decisiones del tribunal europeo nos gustan más

en esta concretamente estrasburgo habla meridianamente claro

se puede aplicar retroactivamente y en detrimento del penado el espíritu de los cambios legislativos realizados después de la comisión de la infracción algo que tiene espíritu de generalidad

algo imperativo algo inmediato que además lleva aparejado el mandato

de la inmediata puesta en libertad y rehabilitación a la demandante inés del río se nos comenta que hay algunas decisiones

menos pero estamos obligados igualmente a acatarlas

le comento también señora llanos hay tres condenas recientes del tribunal europeo de derechos humanos que habla de falta de investigación en caso de torturas

hay tres denuncias tres condenas contra españa

en el caso concreto de la detención incomunicada doktrina hau indarrean

gracias presidenta hablemos claro y digamos las cosas como son hoy el representante de eh bildu ha bajado

y para justificar las acciones criminales de eta esta es la realidad de los hechos y no es la primera vez que ocurre en esta legislatura y por lo tanto algo habrá que hacer

eh bildu insiste en hablar de presos políticos

lo que se está diciendo es que los presos de eta condenados por asesinar a inocentes están encarcelados injustamente

de presos políticos es decir ustedes vuelven tratar de justificar los asesinatos de eta y esto es lo que básicamente ustedes hacen prácticamente todos los días del año y hoy han vuelto a hacerlo

las acciones criminales de eta debería ser motivo de ilegalización

hablar de presos políticos es decir que los presos de eta

encarcelados por asesinar a gente inocente están encarcelados de manera

pretender justificar las acciones criminales de eta ustedes insisto no pueden hablar de derechos humanos ustedes no tienen legitimidad para hablar de derechos humanos ustedes han estado décadas y años justificando

el colmo del cinismo y el resto de partidos políticos se lo debería de decir claramente

otra vez el conjunto de los demócratas deberíamos estar unidos nacionalistas no nacionalistas derecha izquierda foralistas o no foralistas

a ustedes claramente en esta tribuna que ustedes vuelven a pretender justificar

y que ustedes no tienen legitimidad para hablar de derechos humanos porque a día de hoy catorce de marzo de dos mil trece siguen sin condenar las acciones criminales de eta

su historia criminal y siguen sin exigir a la banda terrorista que desaparezca de manera incondicional y para siempre y aquí los demócratas insisto derecha izquierda nacionalistas no nacionalistas deberíamos estar absolutamente

nuestra enmienda de totalidad defendemos la doctrina parot nos parece justa y necesaria y desde luego estamos en contra otra vez del cinismo político

lo decidirá el tribunal de derechos humanos de estrasburgo cuando

no va a conseguir rescribir la historia aquí ha habido

presos políticos hay presos condenados por pertenecer a una banda terrorista por asesinar por cometer actos terroristas

tendrán que pedir disculpas alejarse de la violencia recorrer el camino de la reinserción si quieren pero cada uno asumiendo las responsabilidades de su pasado incluido ustedes y mire en euskadi hay muchos conflictos políticos incluido el conflicto referido al marco jurídico político la diferencia es que todos los demás

y a través del voto y la defensa de nuestras posiciones

y la diferencia con ustedes hasta ahora es que querían resolverlo a través de la imposición

y de asesinar para conseguir ese objetivo ese el conflicto político que ha defendido eta

porque yo le reconozco que ustedes han evolucionado pero tenga la valentía de reconocer

porque lo que se pretendía era a través del asesinato con la justificación de defender un conflicto de querer resolver un problema político que nunca lo ha sido

y hacerlo a través de la imposición y chantaje para imponer un proyecto totalitario

como ya he dicho pretenden simplemente hacer una campaña de agitación una campaña que influya las decisiones que se tienen

a veces con algunas expresiones que a uno le recuerdan preocupaciones del pasado

que se llama xabier alegria que dicen nadie entendería una decisión negativa de estrasburgo

usted ya me entiende cuál es mi preocupación en todo caso quiero insistirle en que

en españa o a nivel internacional que nosotros acataremos y que espero que usted también lo haga está

también en las suyas especialmente porque deberían facilitar a los presos

deberían animar para que se acojan a salidas viables y realistas

acogerse a los caminos de la reinserción para así poder recorrer el camino que les permita reinsertarse en la sociedad y no deberían

de soluciones colectivas porque no las habrá y usted sabe que no las habrá y por lo tanto si siguen alimentando falsas esperanzas de soluciones colectivas simplemente están engañando a los presos

asumir la responsabilidad que ustedes tienen para que los presos puedan acogerse a la legalidad por cierto como han hecho ustedes porque

una contradicción bastante grave que ustedes asuman la legalidad

a que se puedan acoger a esa misma legalidad para recorrer el camino de la reinserción y acabo

siempre que usted quiera y yo voy a aceptar debatir con usted pero tendrá mucha más legitimidad para defender y hablar de derechos humanos

que condena todos los asesinatos todas las extorsiones

gracias señora presidenta después de lo oído hoy aquí

antes de intervenir quiero hacer una petición a la presidenta para que inste al portavoz

a la democracia que es hablar de presos políticos vascos en un estado democrático como el español no hay ningún

están por cometer delitos y hablar de presos políticos es una ofensa al estado democrático de españa por eso solicito a la presidenta

esa expresión que no se puede consentir en democracia eskerrik asko llanos andrea aktan

idatzita geratuko da yo le vuelvo a solicitar

no señora presidenta llanos anderea jarraitu nahi duzu creo que esto es un previo democrático en el que si no

es que creo que esto es un rollo señora presidenta llanos anderea

es la presidenta de esa cámara porque eso en democracia no existe no existe ningún preso político en españa no existe y eso es una ofensa

y usted como presidenta del mismo debiera exigir esa rectificación

sí gracias presidenta y buenos días a todos y a todas

y hoy intervengo en nombre de mi grupo para volver a plantear la postura política de los socialistas a favor del cierre definitivo de la central nuclear de santa maría de garoña creíamos que era algo en lo que ya empezábamos a estar todos de acuerdo

de intentar hacer los trámites necesarios para mantenerla abierta como todos conocemos el pasado dieciséis de diciembre la central de desconectó de la red eléctrica culminando así una parada progresiva

era y es una demanda social respaldada por gran parte de la sociedad y una demanda política planteada en cada una de las instituciones

en esta cámara hemos manifestado casi todos en varias ocasiones el criterio desfavorable a que la central continuara con su actividad hace unas semanas

pero mantiene el cierre que es lo que en este momento nos ocupa y nos importa aunque hay informaciones como he dicho que apuntan a que el gobierno central estaría negociando

al menos hasta dos mil diecinueve de hecho ha manifestado el deseo del gobierno de rajoy a mantener operativa la central más allá de dos mil trece pero esperemos que esta vez sí podamos verla cerrada de forma definitiva

una moción presentada por el grupo juntero bildu sobre este mismo tema y que salió con el respaldo de todos los grupos a excepción del partido popular

se han pronunciado en el mismo sentido y después de muchos años de debate

parece ser una realidad que ya tiene fecha de caducidad a día de hoy sigue estando presente la preocupación por las empresas implicadas

la situación en la que quedarían y quedarán los trabajadores afectados los socialistas vascos entendemos que el punto de partida en esta ocasión es diferente hoy vemos el cierre de la central como una realidad de ahí que la iniciativa original vaya más allá del posicionamiento

así el punto uno pedía la ratificación de los acuerdos alcanzados en esta cámara el punto dos

el punto tres la inclusión de los municipios vascos afectados por la central y el punto cuatro la remisión a los actores implicados reconocemos en la necesidad de abordar el debate energético para futuras generaciones

fórmula pasará por un mix una combinación de fuentes distintas pero que en cualquier caso se dirijan a una progresiva sustitución de fórmulas contaminantes

y limpias que encontraremos en nuestro propio entorno en uno de los últimos debates mantenidos en esta cámara reconocimos que pocas veces se ha mantenido tanta información pública sobre la producción de las centrales nucleares la mayoría de las documentaciones elaboradas por los diferentes entes están al alcance del conocimiento ciudadano

se evitaría invertir en nuevas infraestructuras una buena excusa para retrasar el cierre en estos tiempos se mantendrían trescientos puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos en un momento en el que el paro es una de las mayores preocupaciones ciudadanas

que es lo que generaba esta central seguiría sin producir gases contaminantes

pero también es cierto que el gobierno del señor rajoy ha cerrado todas las líneas de subvenciones a las energías renovables y han quedado muchos proyectos en el aire también en la comunidad autónoma vasca

para reflexionar sobre el futuro energético de nuestro país y porque esta debiera ser una preocupación de todas las fuerzas políticas termino mi intervención alegrándome del acuerdo alcanzado con el grupo eh bildu

a través de esta enmienda entendemos que hemos podido incluir las diferentes aportaciones planteadas por los grupos en las enmiendas parciales presentadas y sin más
esperaré a escuchar a los demás grupos para ver si podemos ampliar el acuerdo nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea zuzenketak aurkeztu

la enmienda a la totalidad que euskal herria bildu ha presentado en relación a la exigencia del cierre definitivo de la central nuclear

está fundamentada en cinco puntos y así quedan reflejados en la enmienda transaccionada en ese cuarto punto estos puntos son recogidos casi en su totalidad en la moción

presentada por bildu y que contó con el apoyo del partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi y por las representantes del grupo mixto ezker batua

fue el partido popular el único grupo que votó en contra euskal herria bilduk egiten duen proposamena

qué entes son los que desde euskal herria bildu consideramos que deben formar parte de dicha comisión

la diputación foral de araba y sus juntas generales y las entidades locales del territorio histórico de araba especialmente los concejos municipios y cuadrillas más próximos a garoña además proponemos que esta comisión sea mixta que exista posibilidad de participación extrainstitucional es decir también puedan formar parte los agentes sociales asociaciones medioambientales los sindicatos y los agentes económicos como la central de garoña no es un caso aislado sino que es un modelo de central similar a otras que hay y ha habido en el resto del mundo consideramos importante contar con la experiencia de organismos internacionales

y con aquellos que ya hayan vivido experiencias similares no solo en relación al cierre de las centrales sino también en los procesos de reactivación económica

que en este espacio intervengan también el csn y las administraciones implicadas del estado español no es momento de perpetuar debates en esta cámara y en otras

este mismo debate se abordó el dos de junio de dos mil seis en esta misma cámara

el veinticuatro de noviembre de dos mil ocho en juntas generales de araba en el mismo sentido y el doce de junio de dos mil nueve también en esta cámara con el mismo resultado esperemos que este ya sea

de nuevo el tema de garoña el debate actual trasciende ya del cierre en opinión de euskal herria bildu y debe ser enfocado en las soluciones y en las claves del desmantelamiento pero además de ello consideramos que se debe dar un debate político sobre el modelo energético y sobre el modelo del supuesto desarrollo un debate que se le hurta a la sociedad beneficiando siempre a quien quiere hacer negocio de la explotación

euskal herria bildu presenta hoy una hoja de ruta para el día después del seis de julio de este año

pueda ser revertida no aceptaremos ninguna negociación con el lobby nuclear representado por nuclenor es decir no aceptaremos ninguna negociación con endesa y con iberdrola

esperemos que otros como el del fracking no deban ver vencerse tras décadas de discusiones sino que nunca más deban realizarse gracias a la prohibición de esta técnica por parte de esta cámara en el corto plazo

en este sentido será clave el desglose del presupuesto que nos debe presentar el gobierno vasco para conocer su voluntad a nivel de política energética

será por una cuestión de futuro por el que se deberá dirigir el debate haciendo para ello una inversión en políticas sostenibles y renovables

la central nuclear de garoña está cerrada físicamente y abierta jurídicamente

ya que ningún organismo público está cumpliendo con sus obligaciones

en caso de inseguridad como es este el caso y el csn tiene que tramitar el cierre si los

y qué casualidad que se cumplen ambas de las condiciones y que lo que sucede es que no hay voluntad política para abordar el cierre definitivo

y energético y que tienen representado también en sus entrañas

hacía varios guiños a nuclenor con el fin de prolongar la vida útil de garoña una vez más otro dato preocupante es la intención de nuclenor de realizar un almacén nuclear temporal en garoña de unos seiscientos metros cuadrados con cinco contenedores al aire libre

tampoco cuál será el tiempo definitivo de ese supuesto almacén temporal y ya veremos si acaba siendo temporal o no

que este sea dentro de poco un asunto que debamos discutir en esta cámara

euskal herria bildu apuesta por la emancipación del modelo consumista neoliberal y en esa lógica apostamos por un modelo energético fuera de la lógica desarrollista

impuesta por el capitalismo para ello resulta indispensable un gobierno público respecto a la gestión de la energía como recurso estratégico

debe dejarse en manos de intereses privados que solo atiendan al incremento del beneficio económico propio en este momento de crisis estructural

urgente abordar desde la planificación pública la transición hacia un modelo energético descarbonizado descentralizado

una política energética liderada necesariamente por los poderes públicos para imposibilitar los desmanes de los intereses privados y sobre todo debates como el que estamos teniendo hoy aquí se circunscriban únicamente a cuestiones técnicas y de seguridad en el cierre de una central nuclear

desde euskal herria bildu dejamos claro que el sector energético debe estar en manos de los poderes públicos

berria eta berehala behar du por ello pedimos que el resto de los grupos se sumen y voten a favor de la enmienda transaccionada y por todo ello cierre y desmantelamiento inmediato de garoña ya eta fracking ez ez hemen

muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios

y muy brevemente puesto que este debate ya lo hemos mantenido en muchas ocasiones en esta cámara yo no sé

santa maría de garoña está obsoleta o está vieja los informes del consejo de seguridad nuclear no dicen eso pero

sí sé por mí mismo es que es este debate el que está viejo obsoleto

absolutamente siete proposiciones no de ley se presentaron en la anterior legislatura ante el pleno ante la comisión y ya el parlamento se ha posicionada sobre esta cuestión durante mucho tiempo muchas veces

instó reinstó al gobierno de españa y parece fíjese usted parece que el gobierno de españa no porque el gobierno de zapatero lo que hizo fue prorrogar la vida de la central nuclear prorrogar cinco años la vida de la central nuclear mire

que ha sido la propia empresa nuclenor la que ha decidido por cuestiones económicas por cuestiones empresariales poner fin a la actividad de la central

ha sido nuclenor y fíjense ustedes si eso es así

eso es lo que previsiblemente va a pasar ahí están las actas señorías no vamos a reproducir argumentos las circunstancias son distintas hoy se prevé un cierre se trabaja en la central con esa previsión empresarial que no es del gusto de los trabajadores pero es así la empresa trabaja en el cierre definitivo paró su actividad de producción energética a finales de diciembre y trabaja en la consideración del cierre

por la propia central nuclear se ha afirmado que se han celebrado reuniones con los representantes de las empresas subcontratadas por nuclenor para que conozcan la situación y se preparen para colaborar en la primera fase del desmantelamiento eso es la situación en la que estamos esa es la situación y ante esta situación otra vez el debate estéril el debate repetitivo el bucle infinito

nuclenor dice que cierra señora rojo no sé

igual el gobierno adopta alguna decisión nuclenor adopta alguna otra decisión que sea distinta de la prevista hoy y entonces presenten ustedes una iniciativa pero hoy por hoy se trabaja por el cierre y por el desmantelamiento y eso ustedes lo saben

diciendo que lo procedente ante el previsible cierre de la central es trabajar por esa segura depresión que

posiblemente una depresión social y por ello nosotros sí que queríamos presentar una enmienda

al gobierno vasco también a que contemplen medidas para beneficiar medidas económicas para beneficiar a los ayuntamientos vascos

nuestra enmienda efectivamente la enmienda está recogida en

pediremos votación separada pero el resto de los puntos señora rojo no votaremos el primero de ellos por coherencia con nuestra actitud nuestros planteamientos

que aquí se han tomado y nuestro planteamiento en relación con ellos la segunda porque nosotros no vamos a hacer

que no ha firmado es decir nosotros el gobierno además de españa tomará las decisiones que deba de tomar en cualquier caso y ahí estarán y en el momento que las tome algunos de ustedes o el grupo parlamentario que lo considere

yo creo que no es precisamente lo más democrático desde nuestro punto de vista se verán las decisiones que un gobierno democrático tome y se podrá actuar

vasca en relación con el seguimiento de desmantelamiento de la central yo creo que no tiene ningún sentido habiendo

así que en ese sentido señora presidenta nosotros pediremos votación separada del punto tres de la enmienda de transacción eskerrik asko

plenario que no contó con nuestro voto y por lo tanto es obvio que no votaremos a favor ni de la propuesta original que ha desaparecido ni de la enmienda de transacción menos en los puntos que

a estos acuerdo plenarios habidos en el pasado nosotros

perfectamente respetable aunque sea ciertamente cansino que haya quien inste al gobierno de españa a cerrar la central nuclear de garoña o que se insista en reiterar la y volver a instar tantas veces como sean necesario al gobierno de españa para que proceda a su inmediato cierre pero ya digo que nosotros no vamos a pedir su cierre

por lo demás efectivamente somos favorables a que los ayuntamientos vascos situados en el área de influencia de la central puedan ser beneficiarios de las medidas que se adopten

se produzca y podríamos ser favorables a que cuando se produzca el desmantelamiento de la central

u otro del proceso de desmantelamiento podamos recabar toda la información que sea precisa y podamos atender de la mejor manera posible a los ciudadanos afectados de ahí

instar al gobierno de españa a mantener las exigencias de seguridad y por tanto las inversiones necesarias para que la central nuclear de santa maría de garoña

funcionando es decir no estamos pidiendo que la central nuclear siga funcionando sino que si sigue funcionando el gobierno de españa mantenga las exigencias

las inversiones necesarias lo que tampoco vamos a hacer es pedir su cierre mientras los técnicos consideren que puede

en la propuesta que hoy nos presenta sobre la situación de garoña se nos propone reafirmarnos en los acuerdos que se alcanzaron ya en este parlamento

y como somos serios y coherentes pues nuestro grupo va a mantener

en apoyar esta iniciativa que solicita el cierre de la central nuclear de garoña no hemos presentado ninguna enmienda por cuanto la propuesta contiene elementos que estaban acordados ya por la mayoría de

algunos de los cuales fue propuesto por el grupo nacionalista vasco y va a seguir apoyando en el día de hoy la propuesta de cierre de la central por las siguientes razones en primer lugar

en segundo lugar porque no ha variado la circunstancia objetiva de la instalación que aconseje ningún tipo de cambio de criterio al respecto la única novedad consiste en que el consejo de administración de nuclenor la sociedad que promueve y que es la propietaria de la instalación

tomó la decisión del cese de la actividad de la central nuclear en principio lo hizo por la incidencia que el denominado impuesto nuclear contenido en la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que entró en vigor el uno de enero pasado suponía para la economía

podía pasar a ser negativa al aplicar este impuesto nosotros en este debate

y este debate como parece que va a haber mayoría que va a apoyar su cierre pues yo me voy a dirigir en especial a los parlamentarios que presuntamente no van a apoyar este cierre decía el señor barrio que él no era consciente de la seguridad o de la antigüedad

tiene cuarenta y siete años y cuarenta y siete años en una tecnología es muy difícil que aguante sin ningún tipo de renovación

hubo también otro hito y es que la seat empezó a hacer el ochocientos cincuenta recordará era un coche que tenía tres metros y medio de longitud que tenía treinta y siete caballos que tenía velocidad máxima de ciento veinticinco kilómetros por hora

dos puertas yo les diría a los parlamentarios que van a votar en contra de garoña

porque el viaje resultaría lento incomodo e inseguro entonces la pregunta es

de la automoción como garoña a la tecnología nuclear algo completamente obsoleto

y viejo y entonces creo que si nadie se fiaría hoy a hacer un viaje en un ochocientos cincuenta tampoco deberíamos confiar en una tecnología que es del año mil novecientos sesenta y seis garoña se inauguro en el setenta y uno pero las primeras obras

luego también quería decir que el debate que tenemos hoy no es un debate sobre la política

de garoña yo conozco mucha gente de voto conservador de valles cercanos a garoña que son favorables a la energía nuclear y también son favorables

esté de acuerdo en el cierre de garoña insisto en que hay gente conservadora

pero también que son favorable al cierre de garoña evidentemente por lo que hemos dicho antes por la antigüedad y por la falta de seguridad la falta de seguridad es consecuencia directa de la antigüedad de las instalaciones

tener en la memoria y en la retina las crudas imágenes de chernobil

ocurrió en chernobil y en fukushima lo que hablemos de garoña puede ser

en otras latitudes entonces hay que considerar que aquí estamos sentados en el parlamento vasco

a cuarenta y cuatro kilómetros trescientos ochenta y cinco metros de la central de garoña

y vitoria gasteiz es algo así como treinta y dos kilómetros por hora

que si una distancia de cuarenta y cuatro kilómetros y el viento va a treinta y dos por hora y ese día

sur suroeste que evidentemente empuja hacia bizkaia y vitoria gasteiz

pues en una hora y diez o en una hora y cuarto evidentemente esa nube tóxica estaría en vitoria y es imposible como todos sabemos

en menos de dos horas a parte que antes de que llegara a vitoria gasteiz la nube tóxica pues se habría posado ya sobre las cabezas de los ochocientos mil habitantes de la cuadrilla alavesa añana

burgaleses de la ciudad de miranda de ebro

una posible situación de emergencia pero evidentemente dado los cuarenta y siete años de uso de la central nuclear

han tenido su recauchutados y sus parches como no puede ser de otra forma creo que es lícito con

un núcleo muy fuerte de habitantes en una ciudad muy cercana con un viento que corre muy fuerte y yo prefiero no imaginármelo pero la imaginación es libre en hora y cuarto puede que hubiera que

algo imposible entonces yo quiero volver a recordar a los parlamentarios que presuntamente hoy

que no estamos hablando de estar en contra de la energía nuclear ese es otro debate hay gente que queremos votar a favor del cierre de garoña porque además de esto

no entiende cómo una tecnología tan antigua tan caduca tan obsoleta y tan vieja como la de garoña que data de hace cuarenta y siete años todavía puede estar en funcionamiento

darles un pequeño tirón de orejas con cariño y con cordialidad a los socialistas porque su punto tres con el que estamos también de acuerdo dicen que el parlamento vasco insta al gobierno de españa al gobierno vasco

sean contemplados como beneficiarios de las medidas que se adopten tras su previsible cierre en la enmienda original del psoe se hablaba solo de instar al gobierno de españa no al gobierno vasco

que en el año dos mil nueve cuando el gobierno de madrid era gobierno socialista

y entre ayuntamientos alaveses estamos de acuerdo en que se incorporen ahora

sí gracias presidenta muy brevemente únicamente para decir al señor barrio y al señor maneiro que no está en este momento que para ser un debate estéril y repetitivo ya damos rollo al debate porque la final no hacemos más que

era el grupo proponente y no es un debate viejo puesto que ayer el señor se pronunció sobre el mismo y bajaba sobre todo para decir que está muy bien que aquí cada uno nos apuntemos tantos en temas que nos gusta mucho debatir cuando nos interesa porque señor barrio

de cada una de las proposiciones que presentan pleno a pleno y que no quiero nombrar porque precisamente no es usted el parlamentario que más debates repetitivos nos trae y no quiero nombra a otros porque tampoco se trata aquí de ofender

pero les diré una cosa menos mal que existe el señor zapatero

porque debate tras debate y punto tras punto le traen a colación

en la agenda política del gobierno de españa el cierre de la central nuclear de santa maría de garoña fueron ustedes los que una vez más pusieron piedras en las ruedas y desde luego un catorce de marzo un tal día como hoy

y menos mal porque sino ustedes algo tenían que haber hecho para inventarlo porque sino a quien le echarían las culpas de todos los males que suceden en este país nada más muchas gracias

mire lo que le digo a la señora rojo que no sé si le fastidia que se lo

zapatero pudo cerrar la central nuclear de santa maría de garoña

prorrogó la vida de santa maría de garoña así que en ese sentido no estoy diciendo nada que no sea la verdad zapatero la pudo cerrar

además sabiendo que el debate iba a seguir abierto en cualquier caso decir que el señor ramírez también me ha emocionado con eso del ochocientos cincuenta mi padre tenía un ochocientos cincuenta

lo recuerdo con cariño pero en lo que afecta a la central nuclear de santa maría de garoña

yo cuando hemos hablado desde mi grupo nos hemos fundamentado siempre en los acuerdos que ha tomado esta cámara en las resoluciones en los informes del consejo de seguridad nuclear y eso no es lo que opine el grupo nacionalista vasco

son informes serios rigurosos que decían lo que decían y ahí

esa es la cuestión también tengo que repetir aquí hay una gran contradicción en el partido nacionalista vasco el partido nacionalista vasco está el pnv político o parlamentario y luego está el pnv económico porque ahora el señor ramírez otra vez nos vuelve a decir el peligro

habitantes de añana los habitantes de miranda pero ustedes no se han preocupado de eso en el consejo de administración de la bbk

ustedes eso ahí nunca han pedido en el consejo de administración

así que esa es la gran contradicción en cualquier caso señora presidenta nosotros

la discusión era repetitiva y era estéril yo creo que nada es estéril y repetitivo mientras no se consigue

que previsiblemente va a ser el gobierno del pp quien va a cerrar garoña lo que pasa es que hay gente que dudamos de esa previsibilidad y que todavía no lo tenemos muy claro sobre todo por las relaciones del ministro de industria de ayer entonces yo lo que digo la esterilidad y la repetición

acabarán cuando se consiga el cierre de garoña pero como todavía no se ha conseguido y como todavía previsiblemente pensamos que puede haber algún movimiento

de cara a que haya otro permiso de explotación pues es por eso por lo que yo creo que está bien que aunque sea

que se presenta este debate en el parlamento vasco pues lo tengamos que votar hasta que consigamos el cierre definitivo porque insisto señor barrio hay gente que no confiamos en esa previsión del cierre ojalá se cumpla

y repetitivo está muy bien que lo votemos otra vez eskerrik asko ramírez escudero jauna

gracias señora presidenta señorías el pasado uno de marzo se sustanció

a esta moción en relación con la recién creada secretaría de paz y convivencia del gobierno vasco nuestro grupo

muy crítico no tanto con la creación de esta estructura dentro del gobierno como con los objetivos y la línea de trabajo que se ha planteado y así se lo trasladamos

volcara sus esfuerzos no en la deslegitimación del terrorismo y en el cumplimiento y desarrollo de la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo sino en coadyuvar a los intentos constantes y

una decisión que las actitudes y las palabras en el día a día y hoy hemos tenido ocasión de poder asistir una vez más más allá de los estatutos de un partido nos demuestran que no ha sido por convicción sino por necesidad y precisamente consideramos que este nuevo escenario no debería suponer una rebaja de las exigencias que a lo largo de estos últimos años han sido el objeto de numerosos acuerdos en este parlamento la más importante desde nuestro punto de vista

y que precisamente solicitamos se aplique y se desarrolle en nuestra moción nada que ver señorías con las declaraciones que están realizando los responsables

que no vienen sino a corroborar nuestros temores las únicas declaraciones han sido en relación con la petición de beneficios penitenciarios

hacia esas personas presentándolas como enfermas o encarcelados por delitos políticos sin sangre esta postura es un claro retroceso

con la deslegitimación del terrorismo y esto señorías nos parece grave

sino de las propias víctimas que manifiestan su temor al percibir un giro en las actitudes que pudieran acabar en un intento de olvido

nos parece un error que nos traslada a tiempos ya superados precisamente por consensos que nos llevaron a aprobar instrumentos tan importantes como

de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo cuya relectura merece la pena para comprender que no es necesario reinventar nada si queremos avanzar en la deslegitimación del terrorismo y en la consecución de la paz libertad y convivencia de la sociedad vasca

se recoge en diferentes artículos la justicia la dignidad la reparación la participación de las víctimas la verdad la memoria y me gustaría detenerme especialmente en el artículo número nueve

libertad y convivencia como derecho de la sociedad vasca porque quizás nos ayuden a entender y reflexionar a cerca de lo que el partido popular

que hoy se pretende poner en marcha así como el contenido del segundo punto de nuestra moción

el uso o amenaza de la fuerza ilegítima para provocar un estado de terror en la ciudadanía en un grupo de personas o en personas particulares con propósitos políticos e injustificables en cualquier circunstancia cualquiera que sean las consideraciones políticas filosóficas ideológicas raciales

para pretender su justificación los poderes públicos vascos en el ámbito de su competencia adoptarán aquellas medidas previstas en el estado democrático de derecho

la seguridad y la igualdad de las personas y de los grupos que se integran sean efectivas y reales

y para ello los poderes públicos vascos velarán por el derecho de las personas a vivir en paz

resolviendo las diferencias sobre cuestiones políticas o de otra índole por medios exclusivamente democráticos excluyendo el uso o amenaza de la fuerza

así como la promoción de valores democráticos en todos los niveles del sistema educativo promoverán el compromiso de los medios de comunicación social en general con los valores democráticos los derechos humanos la paz y la libertad

no tengan cabida en los medios de comunicación público de la comunidad autónoma vasca o que sean recogidos desde una perspectiva editorial comprometida con los valores de una sociedad y democrática y por último pondrán en marcha medidas

defendiendo y promoviendo la legitimación social del estado democrático de derecho y su articulación en normas de convivencia integradora como garantía de nuestras libertades

este fue el consenso y me he limitado a leerlo porque creo que no se puede expresar de una manera más clara de una manera más tajante lo que a lo largo de estos últimos años ha logrado el consenso entre los grupos parlamentarios y entre aquellos

que condenamos la violencia no se puede decir con mejores palabras

esto es lo que tenemos que exigir al gobierno vasco que esta sea la línea que mantenga y desde el partido popular estamos observando desde hace un tiempo cómo esta no es la línea que se está siguiendo cómo vemos que desde el gobierno vasco porque la secretaría

como gobierno vasco se nos está haciendo un llamamiento en otra dirección en esa equidistancia una equidistancia que ya habíamos superado

a otra cosa que a legitimar determinadas actuaciones y determinadas actitudes que se tienen que superar para que realmente estemos en una sociedad

por eso señorías desde la claridad de la moción porque creo que es una moción que no entra en demasiada literatura porque lo que pide es algo muy sencillo en primer lugar

la ley de víctimas del terrorismo y que además se desarrolle y en segundo lugar que se traiga un plan un plan de deslegitimación como dice la ley social política y ética de terrorismo muy sencillo no necesita más literatura

de esta ley todos tenemos claro a que nos estamos refiriendo se han presentado una serie de enmiendas de totalidad

a añadir una literatura que creemos es farragosa que creemos que es la que está llevando a las víctimas del terrorismo a no entender

a que se pueda olvidar o que se pueda dar un testimonio diferente al que ha sido la realidad

que ha estado matando extorsionando y amargándonos la vida durante cuarenta años

la iniciativa pretende poner en valor los consensos poner en valor lo que nos ha unido durante todos estos años cuando se abandonó la equidistancia equidistancia entre las víctimas y sus verdugos cuando se habló claramente de deslegitimación ética social y política

cuando se pusieron en marcha instrumentos tan importantes como el plan de educación y llevar a las aulas a las personas a las víctimas que pudieran dar ahí un testimonio señorías desde nuestro punto de vista viendo estas enmiendas

es una enmienda a la propia ley de víctimas porque no estamos hablando de las mismas cosas porque incluso hasta la enmienda transaccional que yo agradezco a los firmantes tanto del partido socialista de euskadi como el partido nacionalista vasco

haberme trasladado esta enmienda si uno analiza esta enmienda de transacción

no es un lenguaje claro la única claridad del lenguaje es el punto número cuatro

la propuesta del partido popular que es la de aplicar y desarrollar la ley de víctimas del terrorismo

en el lenguaje de la equidistancia y lo que estamos consiguiendo es que nuevamente vayamos a esa piel de elefante de la sociedad vasca en la que se pierda la sensibilidad una sensibilidad que se ha ido trabajando en los últimos años

y que nos hace sentarnos tan tranquilos cuando se habla de presos políticos y señorías esto es lo que tenemos que evitar

está en nuestra responsabilidad en la responsabilidad de los partidos democráticos que fuimos capaces de llegar acuerdos en la legislatura anterior

por supuesto pero que era una base que nos unía a todos y que ahora

no sirven hay que dejarlas de lado para que bildu entre

que así perdemos todos pero sobre todo pierde la sociedad vasca y lo estamos viendo con hechos y con declaraciones de las víctimas que desde luego deberían hacer pensar
a este gobierno muchísimas gracias eskerrik asko quiroga

presidenta nosotros podemos compartir la moción planteada por el grupo popular que acaba de ser defendida por la señora quiroga podemos estar básicamente de acuerdo en lo que se propone en esa moción

acaba de realizar obviamente estamos de acuerdo en que es indispensable instar al gobierno vasco a establecer como objetivo prioritario de acción del gobierno la aplicación y desarrollo de la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo objetivo absolutamente fundamental que debería tener este

gobierno a elaborar en el plazo que corresponda un plan para la deslegitimación ética social y política del terrorismo creo que en esta materia

el objetivo fundamental que debería tener este gobierno y por lo tanto podemos compartir la moción planteada por la señora quiroga sin embargo nosotros hemos más allá nosotros hemos querido ir más allá y así queda reflejado en nuestra enmienda de totalidad el primero de los puntos obviamente no hace sino repetir uno de los planteamientos de la señora quiroga instar al gobierno vasco a establecer como objetivo prioritario de la acción del gobierno el cumplimiento la aplicación el desarrollo

en el segundo de los puntos lo que instamos al gobierno vasco es a elaborar un nuevo plan integral que dé continuidad a los propósitos y objetivos del llamado plan de convivencia democrática y deslegitimación de la violencia que el gobierno socialista equivocadamente paralizó y modificó nosotros pensamos que hay que recuperar lo que se decía en ese plan y por lo tanto este gobierno aunque sabemos que no tiene intención de hacerlo debería poner sobre la mesa un plan que recoja esos propósitos y esos

hasta finales del año dos mil once y el tercero de los puntos es donde digamos se aprecia más

más allá nosotros instamos al gobierno vasco nosotros instamos al lehendakari a cesar al recién nombrado

apropiadas para liderar políticas públicas que tengan como objetivo prioritario la derrota y la disolución incondicional de eta y la atención

enmienda de totalidad instamos al gobierno vasco instamos al lehendakari a elegir

pueda tener como objetivo prioritario todo esto que está señalado

que tengan como objetivo prioritario la derrota y la disolución incondicional de eta en nuestra opinión el equipo elegido por el lehendakari el equipo elegido por el gobierno vasco no cumple los mínimos requisitos para poder esta extraordinaria labor y por eso instamos al gobierno vasco por eso proponemos instar al lehendakari a elegir un nuevo equipo para ello sobre el señor

en esta tribuna nosotros mismos realizamos una pregunta oral al lehendakari sobre el asunto

ocasión no podemos olvidar que el señor jonan fernández fue edil de herri batasuna pero

más que eso lo que nos preocupa es que

digamos que es el símbolo de la negociación política

en ese cargo con esa responsabilidad a una persona de las características de jonan fernández ya digo símbolo de la negociación política con eta

del conflicto político creo que en euskadi hay

este trabajo y por lo tanto en nuestra opinión ni el señor jonan fernández ni el resto del equipo cumplen el perfil necesario para realizar esta extraordinaria

líder de lurraldea sabemos lo que significó aquello la aceptación por parte de las instituciones democráticas la aceptación por parte de determinados partidos políticos de que había que negociar políticamente con eta y por lo tanto elegir a una persona que simboliza eso para liderar lo que deberían ser

las ideas del terrorismo nos parece una muy mala idea y por eso nosotros en esa enmienda de totalidad proponemos su cese y elegir un nuevo

hoy mismo la señora hernando en una entrevista radiofónica no ha hablado de víctimas del terrorismo apenas ha hablado de víctimas del terrorismo

es que las declaraciones del ministro del interior sobre la doctrina parot crean alarma social yo creo que

a otra cosa deberían dedicarse a deslegitimar las ideas de eta deberían dedicarse a deslegitimar las ideas del terrorismo deberían acompañar y mostrarse mucho más cercanas de lo que lo han venido haciendo

en lugar de utilizar palabras pomposas deberíamos ser capaces todos de hablar mucho más claramente y llamar a las cosas porsu nombre por eso digo que cualquier secretaría de paz y convivencia que pueda instaurar este gobierno vasco o el lehendakari debería tener como objetivos prioritarios estos la aplicación y el desarrollo

democrática y deslegitimación de la violencia terrorista y las ideas que han venido sustentando esa actividad terrorista la defensa de la legalidad vigente la defensa de la democracia la defensa de las instituciones

menos de los presos de eta y más de las víctimas del terrorismo no hay que asumir

los amigos de los terroristas hay que hablar menos de la política penitenciaria y de su flexibilización y más de su cumplimiento estricto y riguroso y hay que hacerlo con absoluta claridad y este equipo que el señor lehendakari ha elegido en nuestra opinión no cumple ni de lejos los requisitos para

extraordinario para hacer la rosca a los representantes políticos de eta

estar unidos los demócratas en defender todo aquello que precisamente eta ha pretendido destruir durante décadas la convivencia democrática la legalidad vigente las instituciones democráticas la democracia en definitiva por lo tanto esta es la enmienda de totalidad

indispensable es directa es clara y además de defender la aplicación y el desarrollo de la ley de víctimas además de plantear la necesidad de impulsar un plan de convivencia y deslegitimación del terrorismo lo que pide directamente al gobierno vasco sin disimulos porque así lo creemos es que

y elija uno nuevo es importante que las personas que vayan a realizar esa labor sean personas que se hayan caracterizado

por defender las instituciones democráticas y por defender la democracia insisto sobran las palabras

sobra la equidistancia es el momento de hablar claro y no podemos hacer la rosca

gracias señora presidenta señorías comenzaré mi intervención recordando para dejar claro una vez más que para los socialistas vascos la mejor política antiterrorista

la mejor política para las víctimas del terrorismo la mejor política también para avanzar

es la que se hace sustentada sobre sólidos valores éticos y democráticos la que se hace sobre memoria verdad y justicia pero también la que se desarrolla a través del máximo diálogo buscando el máximo consenso entre todos por eso los socialistas siempre en estas políticas hemos buscado el diálogo

lo hicimos cuando estábamos en la oposición cuando estábamos en el gobierno y ahora también cuando estamos nuevamente en la oposición nosotros nos empeñamos en que hubiera consenso cuando propusimos el pacto por las libertades y contra el terrorismo para juntos

buscamos diálogo y consenso cuando propusimos los dictámenes de la ponencia de víctimas en este parlamento

la lucha contra los espacios de impunidad la deslegitimación ética política y social contará con el máximo respaldo institucional político y social buscamos acuerdos y consensos para poner en marcha el día de la memoria el mapa de la memoria

la presencia de las víctimas para dar testimonio en las aulas y educar en valores éticos y democráticos

podría poner muchos ejemplos pero también uno reciente diálogo y acuerdo para impulsar la ponencia de paz y convivencia en la legislatura pasada y también diálogo y acuerdo en esta a poner en marcha esa ponencia porque estamos convencidos que ese es el mejor camino para avanzar en lo que todavía es un objetivo prioritario que eta desaparezca definitivamente y poder avanzar y consolidar la paz la convivencia

que nadie espere de nosotros confrontación y bronca en el debate de estas políticas

posicionamientos éticos y democráticos claros nosotros siempre fijaremos nuestra posición también lo haremos en la ponencia y convivencia y dicho esto quiero manifestar la preocupación de mi grupo por lo que empieza a ser ya una proliferación de

que nos llevan a un debate permanente que en muchos casos lejos de servir para buscar acuerdo y consensos lo que

aceptamos las legítimas discrepancias pero para avanzar con eficacia convivencia y libertad nos parece insisto que es mejor buscar acuerdos y creo que además hay que hacerlo en sintonía con lo que piensa y opina la sociedad vasca el

da un dato muy significativo solo el tres por ciento de la ciudadanía considera que el terrorismo

la sociedad vasca una sociedad que está más preocupada por el desempleo por la corrupción por los problemas de violencia y esto no pasaba hace dos años

deberemos tener en cuenta porque si no podemos correr el riesgo de que la ciudadanía vaya por delante de los representantes políticos o institucionales y eso sería una mala situación por ello en nombre de los socialistas vascos apelo a la responsabilidad de todos para que

a las preocupaciones de la ciudadanía y evitemos la proliferación no solo de debates sino de foros reuniones y otros instrumentos que lo único que hacen es generar confusión y no responder a las preocupaciones que tiene el conjunto de la ciudadanía

yo insistiré una vez más que la declaración por parte de eta en la que abandonaba todas las actividades terroristas marca un antes y un después y que

abre un nuevo tiempo en euskadi un tiempo en el que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para conseguir que eta desaparezca definitivamente

y la convivencia y creo que el hecho de que quienes amparaban y justificaban la violencia terrorista con

y a veces con actitudes incomprensibles hayan tomado la decisión de apostar por la política alejándose de la violencia es también

tenemos que seguir siendo exigentes todos con ellos sí desde luego los socialistas lo vamos a ser porque no queremos que en ningún caso se pueda equiparar responsabilidades cada uno tiene que asumir las responsabilidades de su pasado

para nosotros en tres pilares fundamentales verdad democracia y justicia para que nadie en el futuro pretenda reinterpretar el pasado rescribir la historia y lo que es peor pueda tener justificación

una vez más hemos intentado buscar consenso con el debate que hoy nos trae aquí

reconozco que nos hubiera gustado que otros grupos de la cámara también

espero que en todo caso esta enmienda transaccional sea solo el comienzo de un camino en el que en el futuro podamos encontrarnos para buscar nuevos consensos y más acuerdos esa es la voluntad que va a guiar el trabajo de los socialistas pero en todo caso la enmienda transaccional

la enmienda es clara tanto en lo que hace referencia al suelo ético y democrático del que partimos como a las exigencias que le hacemos al gobierno vasco y es así porque entre otras cosas parte del suelo ético y democrático que acordamos todos

y a partir de ahí va exigiendo al gobierno vasco que haga un plan de paz y convivencia y que lo traiga a este parlamento para su debate establece que ese plan tiene que conseguir y contener ejes fundamentales como son avanzar en la política de memoria verdad justicia y solidaridad sin equiparar

establece que es necesario trabajar como objetivo prioritario para conseguir que eta desaparezca definitivamente y consolidar la paz la libertad y la convivencia y que

desde el más escrupuloso debate y comportamiento democrático

para que todos podamos defender proyectos democráticos y que estos puedan convivir y debatir con normalidad

que el gobierno tiene que seguir aplicando y desarrollando la ley de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo y así mismo también se mandata al gobierno para continuar desarrollando la normativa necesaria para el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneración de derechos humanos acabo señorías todos tenemos que trabajar para conseguir que eta desaparezca definitivamente

pero no deberíamos pasarnos de vueltas con debates y más debates y con foros y más foros que puedan contribuir de hecho están contribuyendo a generar simplemente confusión del conjunto de la ciudadanía tenemos que ser capaces

tenemos que ser conscientes de que el terrorismo ha desaparecido y que hay que mirar al futuro sin olvidar el pasado

y que aún con generosidad tenemos que ser muy exigentes en que todos aquellos que quieran construir el futuro conjuntamente con todos nosotros lo hagan sobre bases sólidas éticas y democráticas y sobre comportamientos escrupulosos respecto a las reglas del juego y a la legalidad